se emilina producido y o elaborado en la comunidad autónoma de

eta aurrerago eransten da el régimen vasco de producción alimentaria permite utilizar el distintivo de calidad identificativo

artesanía alimentaria vasca a todos los operadores de otros estados miembros que se sometan a régimen previsto en el presente decreto a todos los operadores de otros estado miembro beraz ekoizpena

a todas las instituciones y entidades representantes necesarias e interesadas en estos aspectos además

emakunde la dirección de política lingüística la dirección de salud administración

es decir todas las entidades que tienen que remitir sus informes así como con la oficina de control económico y con

se ha ido dando respuesta a todas las alegaciones que con relación a este proyecto de decreto se han hecho llegar desde diferentes entidades

al que usted hacía referencia del consejo económico y social por el cual ha solicitado usted

una defensa del producto autóctono artesanal de euskadi y nos merece todo el respeto no además compartimos muchas de las cosas que ahí se argumentan

además de que somos totalmente respetuosos con un organismo como el consejo económico y social con sus opiniones y argumentaciones y con todo el resto de alegaciones referidas

tenemos que atenernos a un mercado en el que nos encontramos que es el mercado de la unión europea y no podemos saltar por encima de la normativa europea

un dictamen que es de carácter preceptivo y así lo entendemos

el gobierno vasco tiene que acatar una normativa superior que es la normativa europea en este y en otros muchos casos y por tanto estamos procediendo a continuar

de acuerdo con la reglamentación comunitaria ya que la unión europea es en este caso quien es competente en esta materia y el gobierno vasco asume con seriedad y rigor las competencias que sean tanto locales como nacionales en nuestro caso como supranacionales como de la unión europea

y hacer caso en todo lo posible a lo que

sin embargo puesto que formamos parte de la unión europea continuaremos tramitando el reglamento tal como se encuentra en este momento haciendo especial referencia

de las producciones artesanales en cada uno de los sectores

kontra zegoela la modificación de la producción artesanal posibilitará que producto alimentario foráneo pueda ser calificado como artesano

popular hace referencia al servicio de inspección técnica de vehículos en irun y urnieta

representantes del comité de empresa de los trabajadores de los centros de inspección técnica de vehículos

nos comunicaron cómo están en huelga desde el quince de junio y por lo tanto el servicio se presta de una manera irregular con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos del entorno

prestado por empresas privadas mediante adjudicación en el año

septiembre del dos mil trece donde usted

ha aplicado de alguna manera puesto que ya existe literatura suficiente en esta cámara pero sí lo que solicitamos respuesta a la señora consejera qué actuaciones se está llevando a cabo el gobierno su departamento para reestablecer el servicio de inspección técnica de vehículos en los centros de urnieta e irun

el servicio de las itvs efectivamente es una concesión del departamento de desarrollo económico y competitividad el conflicto que ahora vivimos es un conflicto de carácter laboral

puesto que la presente huelga se inició en el verano de dos mil trece pero que ya la pasada legislatura se produjo una situación bastante similar e incluso más grave el catorce de octubre de dos mil nueve comenzaron unas huelgas parciales y

y a partir de ese momento fueron además una huelga indefinida hasta junio de dos mil diez es decir un conflicto que supuso el cierre total de dos estaciones justo las de urnieta y las de irun y que se acompañaron además con amenazas

el actual conflicto empezó el dieciocho de junio de dos mil trece y se inició también con algunos paros parciales exactamente igual que en el dos mil doce a día de hoy la planta

y la de irun se encuentra como usted sin duda conoce parcialmente abierta a un cuarenta por ciento de su capacidad aproximadamente

los veintinueve trabajadores veinticinco secundan la huelga mientras que en irun son aproximadamente la mitad

a través de tanto nuestro departamento como el departamento de trabajo se han mantenido múltiples reuniones

facilitando la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a esta huelga se han celebrado

puesto que se trata de un conflicto laboral evidentemente el gobierno vasco respeta el derecho a la huelga pero al mismo tiempo respeta la posición de la empresa

tenemos hoy la información debido a todas las reuniones que hemos celebrado de que se están acercando posturas y esperamos en breve

en la cuantía de los incrementos salariales se han acercado posturas

poder terminar con la huelga lo más brevemente posible eskerrik asko tapia

no es nueva esta situación ya la conocemos y además conocemos las consecuencias que una huelga de este tipo tiene para un servicio como es el de la inspección técnica de vehículos

urnieta que se han tenido que desplazar a otros centros para las inspecciones principalmente a navarra a los centros que la misma empresa de irún tiene próximos ya en la comunidad de navarra

pueden hacer cita previa horas de espera donde la empresa recupera parte del negocio que

económica no preocupante sino ciertamente cómoda pero el perjuicio es para los ciudadanos de gipuzkoa

esto tiene otros efectos la administración está dejando de ingresar creo yo el canon que no se hace en gipuzkoa en la comunidad autónoma y se hace fuera por lo tanto tenemos una pérdida económica y además la diputación de gipuzkoa

por lo tanto es repercusión para los ciudadanos y repercusión para las arcas públicas lo realmente serio es que se está poniendo en riesgo la seguridad vial por el porcentaje de vehículos que están circulando sin hacer la revisión en tiempo y de la manera adecuada los usuarios tienen que desplazarse mucho más

y si hablamos de un servicio público obligatorio como decía competencia de esta comunidad autónoma en una materia tan delicada como es la seguridad de vehículos

concesión de la administración competente está claro que ustedes tienen algo que decir no podrán entrar en el conflicto

los pliegos de condiciones de la adjudicación hay cosas que no se cumplen

un servicio cerrado de estas características durante tanto tiempo nos preocupa sé que se han reunido y los trabajadores así nos dijeron que desde el cuatro de octubre están teniendo reuniones pero es que son seis meses y medio de cierre de urnieta

y la de irún trabajando a medio gas por lo tanto señora consejera

como dice usted este conflicto acabe pronto pero es que

de manera casi periódica este conflicto por lo tanto

mila esker presidente anderea estoy de acuerdo con usted señora lópez de ocariz en que

que se generan perjuicios pero hemos analizado por una parte la posibilidad de establecer servicios mínimos como servicio público y es imposible y por otra parte

al cincuenta por ciento y bergara se encuentran abiertas al público y prestan su servicio el servicio público está garantizado otra cosa es que con mayores dificultades y con eso estoy de acuerdo con usted las estaciones

urnieta han sido objeto de las auditorias de control anual y cuatrimestral que corresponde como consecuencia de la concesión y no se han detectado

como dice es una concesión pública sin embargo el canon que se al gobierno vasco como consecuencia de la concesión no se ha visto afectado lo que sí estoy de acuerdo es que evidentemente las arcas públicas en la diputación foral de gipuzkoa se habrán visto afectadas

para conseguir que esto se termine cuanto antes y como usted bien dice no se vuelva a repetir muchas gracias

gracias presidenta y buenos días a todos señora consejera estamos asistiendo en los últimos meses a un baile de decisiones por parte del gobierno de españa relativas
a la energía un baile que sobre todo va más allá de proclamas y buenas intenciones

casi el doble en el fijo de la luz en el último año y de manera indeterminado en un futuro inmediato tanto en luz como en gas

en realidad encarecen los costes de todos con el agravante de que seguimos con nula claridad en las facturas y de que esas medidas están en contra de todo criterio que defienda la eficiencia

en todo este baile no hemos escuchado ni una sola palabra del gobierno vasco ante un asunto que afecta a más de dos millónes de vascos sabemos del único partido que apoya a este gobierno

a cambio de lo que se prestó a difuminar la soledad del pp en materia energética

y sabemos que ante el debate que hemos propuesto sobre pobreza energética

porque por circunstancias sobre venidas no pueda pagar la factura el partido que presume de nacionalista dice que de eso de ocupe el gobierno de españa que nosotros ya contamos con nuestra rgi o con nuestras aes para ello

que hay a quien le cortan la luz todos los días así que a diferencia de otros gobiernos autonómicos el de euskadi se cruza de brazos y calla por eso señora consejera le preguntamos

para garantizar que los ciudadanos de euskadi no sigan sufriendo brutales subidas en sus facturas energéticas

está hecha desde el punto de vista puramente economicista de tratar de reducir el déficit tarifario y no atender bajo ningún concepto ni a una regulación desde el punto de vista eléctrico ni desde el punto de vista de la tarifa que sufrimos todos nosotros sin embargo

no sigan sufriendo brutales subidas en sus facturas pero resulta que no son solo los ciudadanos y ciudadanas vascas quienes sufren estas consecuencias

porque es una regulación del estado en concreto afecta a todos aquellos consumidores no solo ciudadanos y ciudadanas en baja tensión

el gobierno vasco en esta materia no tiene ninguna competencia como usted bien sabe la determinación de los precios y peajes corresponden a la administración general del estado y no es que nos queramos ni poner de perfil ni salir hacia otro lado pero es así

sería bueno que ustedes lo plantearan en la cámara correspondiente desde luego como gobierno vasco estamos haciendo lo que tenemos que hacer

aclarar que el impacto de esta propuesta en la metodología de lo que se denomina cálculo de precios voluntarios

no se circunscribe solo ha ciudadanos vascos tal como apunta sino a todos los consumidores eléctricos entre los que se incluye

una parte muy importante y una vez aclarado este aspecto señalar que en este momento la última de las gestiones realizadas por el gobierno

la de analizar y enviar las correspondientes alegaciones que después continuaremos comentándolas en privado y en reuniones privadas con el ministerio pero las alegaciones correspondientes a la orden que está desarrollando esta metodología de cálculo que es con lo que como gobierno tenemos que hacer por otra parte

desde el gobierno vasco se viene oportunamente trabajando en todos

a esta ley general que después se va desarrollando en órdenes y que se va desarrollando en medidas concretas a la que nos vamos oponiendo y a la que vamos haciendo el trabajo que hay que hacer quiero recordar en ese sentido que a finales de dos mil trece también presentamos al ministerio un informe que evaluaba el impacto sobre la industria y asimismo lo haremos en el caso de los ciudadanos

dieciocho de febrero es decir esta misma semana por tanto el gobierno como tal hace las tareas que tiene que hacer realiza todas las actividades y todas

y convenientes ahora bien se trata insisto de una capacidad

su actitud y medidas adicionales como usted me solicita a mí sin ninguna competencia muchas gracias eskerrik asko tapia andrea rojo andrea zurea da hitza

gracias presidenta hablo de los ciudadanos vascos porque me he dirigido al gobierno vasco los socialistas en el congreso de los diputados no han hecho una sino varias iniciativas
y en las próximas semanas presentarán la iniciativa sobre pobreza energética como ya han anunciado

porque el gobierno vasco podría hacer muchas cosas y no lo está haciendo hace un par de semanas el lehendakari se reunió con el presidente del gobierno asumimos la discreción que se quiera plantear en las relaciones políticas pero a los socialistas nos gustaría saber

a todas ellas a las vascas y a las españolas y nosotros creemos que la deriva energética a

desde el dos mil once según el partido nacionalista vasco ha presumido muchas veces la señora zenarruzabeitia es miembro de la antigua comisión nacional de energía y actual órgano superregulador

vicelehendakari del gobierno haya fijado ninguna posición con respecto a la situación de pobreza energética a la que se está llevando con esas decisiones

sobre este asunto seguro que todos hemos podido hacer más cosas en cualquier momento seguro y desde luego no voy a decir que no cuando nosotros gobernábamos en españa y usted era diputada

hablamos de hoy veintiuno de febrero de dos mil catorce hablamos de decisiones que están lastrando la economía de las empresas y de los hogares

nos queda claro que parece que poco van a hacer porque las competencias son de otros los socialistas estamos dispuestos a abordar todos los aspectos referidos al suministro energético y a las garantías de los ciudadanos y en unos días fijaremos posición en esta cámara por las posiciones fijadas en las enmiendas presentadas

sí pero también desde aquí desde lo que podamos hacer nosotros desde la búsqueda de todos los resquicios legales

podamos contar con el compromiso del gobierno a través del único grupo que le apoya para ofrecer respuesta a quienes hoy están pensando
si podrán afrontar el próximo recibo de la luz nada más eskerrik asko rojo andrea

mila esker señora rojo la materia competencial este gobierno la respeta siempre la respeta siempre en un sentido y en el otro

y además de fijar posición que es relativamente sencillo nosotros adoptamos medidas y actuamos allá dónde tenemos que actuar hacemos las correspondientes alegaciones y trabajamos mano a mano para conseguir lo mejor ahora las medidas paliativas en muchos casos no son suficientes y hay que atacarlo previamente es decir hay que trabajar para que esa orden esos decretos y esas leyes no salgan como están saliendo ese es nuestro objetivo
lo paliativo no es suficiente eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta señor consejero el pasado

de febrero fue posible cerrar un acuerdo en el consejo vasco de finanzas

de dos mil trece y fijar definitivamente las aportaciones de las diputaciones forales a las arcas del gobierno vasco en aplicación de la llamada

polémica y en virtud de un acuerdo que incluye la aplicación de la llamada ley de aportaciones y la compensación de diez millónes de euros que el gobierno vasco

una solución que algunos partidos políticos hemos calificado como chapuza más allá del acuerdo alcanzado

por el mismo se han puesto de nuevo de manifiesto las debilidades del sistema vasco el cual provocará más pronto que tarde si no se actualiza si no se corrige si no se moderniza si no se toman medidas nuevas polémicas y nuevos enfrentamientos territoriales que nosotros en todo caso queremos evitar en nuestra opinión el gobierno vasco ya debería estar trabajando en modernizar el entramado institucional vasco

y también el modo en que se distribuyen los fondos entre las distintas instituciones vascas habría una inmensa batería de modificaciones a realizar digamos que algunas en el corto plazo como puede ser la actualización de la ley de aportaciones y otras en el medio plazo actualización del entramado que sabemos que el gobierno vasco descarta pero que en todo caso nosotros seguimos manteniendo como uno de los objetivos a alcanzar

este tipo de enfrentamientos y otros muchos creo que están evidenciando en los últimos tiempos especialmente que la modificación de este entramado es absolutamente imprescindible más allá de foralismos que están fuera de la realidad y que son antiguos pero

niegue con la cabeza la polémica viene de atrás por las incorrecciones

de la ley de aportaciones y por determinadas circunstancias adicionales que van surgiendo en este caso por la actualización de balances pero

nuevas polémicas y nuevos enfrentamientos territoriales

seguro que habrá nuevas polémicas y nuevas luchas institucionales luchas territoriales y luchas partidarias porque tenemos el sistema que tenemos

es que debe articularse todos los mecanismos necesarios para cambiar esta realidad no queremos soliviantar las luchas territoriales

de los pocos partidos políticos que no entran en esas luchas territoriales que defendemos las mismas ideas en cualquier parte de euskadi en cualquier parte de españa es más justo todo lo contrario queremos evitar esos enfrentamientos que no benefician absolutamente a nadie queremos alcanzar

racional eficiente entendible y transparente por lo tanto yo creo que habría dos cosas que realizar por un lado

a día de hoy cada diputación aporta al gobierno vasco no en función de lo que recaudas sino por el peso relativo de su territorio en la economía vasca este sistema es claramente mejorable y así lo han reivindicado determinados cargos públicos y distintos partidos políticos es claramente

qué es lo que plantea en esta cuestión el gobierno vasco y por otro lado la modernización del entramado que nos plantea continuos problemas prácticamente

en euskadi los cuatro parlamentos los cuatro gobiernos las tres haciendas el hecho de que las diputaciones forales recauden y el gobierno vasco gaste el modo en que se distribuyen los ingresos de las diputaciones forales

reales que los estamos viendo permanentemente que soliviantan los enfrentamientos territoriales en la desigualdad parece claro que la fórmula actual que se aplica para calcular el porcentaje de pago al gobierno por parte de las diputaciones tiene fallos estructurales que provocan un grave desequilibrio económico y habría por lo tanto que rehacer esta fórmula

y la capacidad recaudatoria para tratar de evitar estos desequilibrios yo quería preguntarle señor consejero cuál sería su fórmula el gobierno vasco debe defender los intereses de todos y la máxima igualdad posible en el escenario plantear sin miedo todos los cambios necesarios para que estos enfrentamientos territoriales no vuelvan a producirse en fin esto es por lo que nosotros le interpelamos señor consejero por las medidas que piensa tomar el gobierno vasco para actualizar el sistema actual de reparto de los flujos de dinero
entre las distintas instituciones vascas gracias eskerrik asko

es lo que tenemos en euskadi un lío considerable con nuestro entramado institucional que efectivamente conocemos cuáles son sus peculiaridades y como funciona y la necesidad de que distintos partidos políticos distintas instituciones puedan ponerse de acuerdo acordar determinadas cuestiones que son interés general del conjunto de los ciudadanos sabemos cuál es el entramado y a nosotros este entramado nos parece

pero no porque no lo entendamos entendemos cómo funciona nos parece lioso porque a la hora de tomar determinadas decisiones nos encontramos con distintos

las decisiones que mejor y más interesarían al conjunto de los ciudadanos ya digo que conocemos el sistema sabemos cómo funciona usted suele repetir habitualmente que es el modelo que tenemos que es el modelo que nos hemos dado pero nosotros pensamos que ese modelo puede y debería cambiarse

radicalmente pero en el corto plazo y asumiendo el sistema que tenemos qué cambios propondría usted para que

qué cambios propondría el gobierno vasco en la ley de aportaciones

en esta ley o creen más bien que no hay nada que cambiar cuáles serían según usted esos asuntos que habría o que deberían ser

la ley de aportaciones usted lo ha explicado no le parece que habría que tener en cuenta las peculiaridades de cada territorio como el tamaño la estructura productiva

algunos diputados generales han planteado piensa usted que esta es una posibilidad la descarta o piensa que el objetivo fundamental debe ser

poder poner determinados parches para corregir la situación y contentar a cada una de las instituciones este es el asunto de fondo yo creo señor consejero que el último lío porque es un lío el último lío habido en el consejo vasco de finanzas vuelve a demostrar el lío que tenemos

creo que vuelve a demostrar que las diputaciones forales sobran y que la arquitectura institucional de euskadi es enormemente problemática irracional y absurda porque instaura la opacidad y el enredo

a los ciudadanos en fin el entramado institucional vasco y sus cuatro parlamentos y sus tres diputaciones y sus cuatro gobiernos y sus tres haciendas y sus tres políticas fiscales y sus tres planes separados contra el fraude que deben luego incorporarse a uno conjunto que no termina de hacer y su consejo vasco de finanzas y su

y su ley de aportaciones y su ley de territorios históricos dibujan en nuestra opinión un panorama absolutamente opaco lioso derrochador ineficaz

pueden atreverse a seguir defendiendo a día de hoy en el siglo

en fin el último ridículo es el enredo y la chapuza de la última reunión del consejo vasco de finanzas pero se están produciendo líos permanentes como consecuencia de este entramado por lo tanto yo creo que lo debe hacerse en primer lugar

de la ley de aportaciones y que el gobierno vasco nos plantee aquí cuál sería su propuesta para reformar esta ley de aportaciones

reformar en profundidad el entramado institucional vasco una medida habría que tomarla de manera inminente de manera urgente andamos ya tarde de hecho como es la renovación la modificación de la ley de aportaciones lo otro habría que hacer cuanto antes en nuestra opinión pero en todo caso es también indispensable ambas cosas

modificar la ley de aportaciones sabiendo cuál es el entramado actual pero por otro lado seguir dando pasos o mejor dicho empezar a dar pasos para racionalizar institucional que tenemos que no sea tan difícil impulsar políticas que beneficien por igual al conjunto de los ciudadanos vascos en definitiva esto es lo que según nosotros

presidenta señoras y señores parlamentarios señores miembros del gobierno señora

bueno vamos a hablar un poco de la introducción de esta interpelación

las responsabilidades del gobierno en el futuro en relación con la financiación de algo tan importante como es el deporte

en una determinada situación como fue la de la comisión de cultura de este parlamento pero a la vez entender que

la financiación del deporte la relación con las federaciones y el planteamiento en conjunto sobre la cuestión

y en la sustanciación de la proposición no de ley referida al modelo de financiación del deporte fueron

popular y el grupo nacionalistas vascos decía lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en coordinación con las instituciones con competencias en materia deportiva presente a lo largo

vasca así como la mejor distribución posible de los recursos de que dispone para el deporte siempre en la búsqueda del mayor consenso posible ahí está

y las entidades deportivas el mejor modelo posible de financiación pública al deporte

para ello desarrollen la colaboración y coordinación con las diputaciones emprendiendo una reflexión conjunta y redactando un informe en el plazo de cuatro meses el citado informe recogerá por un lado el diagnóstico de la situación económica de las diversas entidades deportivas de todas las categorías y

de las entidades y las reflexiones obtenidas de la reflexión conjunta interinstitucional y sus conclusiones podemos ver que las dos propuestas son prácticamente iguales van en el mismo sentido y el hecho de que no se haya aprobado ningún texto común al final

que es una necesidad pendiente en relación con la financiación del deporte esta interpelación podrá dar pie a una moción seguramente y podrá subsanar esa especie

después de ese pequeño fracaso parlamentario es bueno

por el tema estratégico de la financiación pública en este caso pero también de la búsqueda del conjunto de financiación público privada del deporte y sus modelos hay una cosa muy clara federaciones deportivas

unión de federaciones clubes instituciones públicas fundaciones del deporte escuelas del deporte conforman un complejo colectivo que requiere una importante reflexión estratégica en relación con el aprovechamiento de los recursos públicos y la eficacia del gasto público y también estratégicamente lo contemplado de los recursos y de la financiación privada

la ley catorce barra mil novecientos noventa y ocho del deporte del país vasco es clara también

cuando habla del gobierno vasco de instituciones comunes en el título

su apartado de que corresponde a las instituciones comunes de la comunidad autónoma vasca el ejercicio de la competencia de aprobar las federaciones deportivas así como su asistencia financiación e intervención y control para garantizar el cumplimiento de sus fines públicos estamos hablando de fines públicos sin menoscabo de su actividad privada efectivamente ahí está

la adopción de medidas que incentiven el patrocinio privado del deporte como complemento de la actuación pública hay un elemento también estratégico sobre el que reflexionar entre todos entre federaciones pero también entre instituciones

la asistencia técnica y ayuda económica a clubes y demás asociaciones deportivas domiciliadas en su territorio concediendo

la aprobación de las federaciones deportivas territoriales como financiación es decir la palabra financiación y el elemento financiación en todo lo que tiene que ser una actividad

ahí están las cuestiones planteadas también los municipios desde luego forman parte de todo ese entramado que de alguna manera financia públicamente

vasca de deportes en relación con las nuevas formas de financiación de las federaciones deportivas es decir es algo donde también el entramado deportivo está preocupado porque tenemos que decir porque es así las subvenciones o las aportaciones públicas

de federaciones deportivas ha ido bajando en los últimos

hace falta que se replanteen nuevas fórmulas de financiación o de gestión

la política deportiva en este país en definitiva es una interpelación para tratar de conocer para tratar

lo que va a ser el futuro de la financiación del deporte por parte de las instituciones públicas y en ese sentido

de financiación públicas del deporte para los próximos años muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

en relación a la financiación del deporte por parte de las instituciones públicas esta aprobación general se está diluyendo

el debate en torno a la financiación pública del deporte fundamentalmente en el ámbito profesional está cada vez más extendido en la sociedad cabe recordar en este sentido

que dice así la obtención de recursos económicos para el deporte debe realizarse a través de una financiación desde el sector privado que complemente la acción pública así pues

cuál debe ser el modelo de financiación de la actividad deportiva y cuál su fuente de ingresos lo cierto es que no podemos permitir que la financiación de la actividad deportiva en su conjunto recaiga única y exclusivamente en la administración pública menos aún

profesionalizados del deporte que aunque es cierto que han sufrido las consecuencias de la actual crisis no son ni deben ser un elemento aislado del resto de la sociedad es decir el deporte al igual que otros sectores y ámbitos de diversa índole

debe estar sujeto también a las mismas directrices políticas precisamente por ello una de las primeras medidas adoptadas por este ejecutivo en el ámbito deportivo

desde los diversos estamentos de la administración esta medida tiene como objetivo tratar de reorganizar y unificar dichas ayudas con el fin de que estas

es lo que reclama la ciudadanía es lo que requiere la sociedad en una situación que considera complicada no solo para el ámbito de deporte insisto sino para cualquier sector o actividad

en consecuencia el gobierno vasco ha establecido una política de financiación del deporte

que responden a los principios de objetividad transparencia igualdad no discriminación y publicidad dichas convocatorias están destinadas a financiar

por otro lado la participación en competiciones deportivas oficiales y de ámbito y carácter internacional en categoría absoluta

la organización de competiciones deportivas de alto nivel y solamente de manera extraordinaria y con carácter excepcional se podrán conceder subvenciones para celebrar eventos

dicho interés será analizado o valorado en función de la proyección que puede suponer un evento deportivo para la imagen de euskadi y su cultura en el exterior de manera paralela estamos trabajando en un nuevo plan de actuación para el apoyo del deporte de alto nivel a través de la fundación euskadi kirola

la adopción de una serie de medidas para la reordenación y optimización de los recursos destinados al fomento del deporte de alto nivel

destinadas a este segmento del deporte vasco así pues señor barrio estamos trabajando para reordenar y optimizar los recursos existentes y establecer un nuevo esquema para la prestación de ayudas al deporte basado en criterios objetivos de transparencia e igualdad

pero nuestra labor debe ir más allá de las ayudas económicas que podamos otorgar al deporte

extender y socializar la práctica deportiva al tiempo que se promueve el deporte de alto nivel

garantizando unas infraestructuras y equipamientos deportivos sostenibles y de calidad para la consecución de dicho objetivo existe un elemento clave e indispensable la coordinación esa coordinación por la que abogaban precisamente las dos enmiendas transaccionales

y que sin embargo aunque resulte irónico no pudieron ser aprobadas por no alcanzar el necesario consenso he de decirle señor barrio que estoy de acuerdo con usted

somos plenamente conscientes de que resulta necesario conseguir una adecuada coordinación del conjunto de los agentes principales tanto públicos como privados ello permitirá organizar un sistema vasco del deporte capaz de sacar al máximo rendimiento

en esa línea es un tema ciertamente importante no es un tema menor

porque tiene que ver con su estímulo una sociedad que practica deporte es una sociedad

de salud y efectivamente hacia ahí tenemos que apuntar hacia una sociedad más sana va a ser bueno para muchas cosas en este país esperemos que

no ya ese debate sino concretar y materializar esa necesidad de encargar al gobierno algún tipo de documento estratégico en relación con esta cuestión yo me refería antes a los presupuestos y efectivamente al deporte a la federación o a lo que es ese estímulo público

tres millónes de euros al deporte que es muy importante que es uno de los pilares de muchas cosas en las sociedades modernas

de euros a las orquestas sinfónicas que también son muy importantes hay catorce coma cinco millónes

que falle algo hay que hacer mejor hay que compensar

privada que seguramente habrá que estimular pero también serán instituciones públicas quienes tengan que darle ese apoyo también

del apoyo a quienes contribuyan desde un ámbito privado a también a la práctica deportiva hay cuestiones que se han tratado en ese reciente curso

aludido antes de la escuela vasca del deporte redimensionamiento federativo la colaboración público privada

como la cuestión de las licencias bueno hay importantes cuestiones en las que tratar que afectan a ese tema de la financiación por eso entendemos que va a ser interesante

un documento que desde luego apunte en ese sentido es decir

la coordinación y la perfección en esas políticas de estímulo público

menos recursos o sea aparte de las cuestiones que hemos planteado antes lo que hemos dicho antes de redimensionamiento o colaboración o fusión o mecenazgo pues mejores ideas en relación con estas cuestiones

que hay que estimular y que tenemos que estar pendientes como decía antes recientemente el tema de la financiación federativa se ha tratado

en las federaciones deportivas con esas interesantes aportaciones en relación con la subvención pública la licencia

importantes entendemos que el gobierno vasco se debe de concentrar también
ayudar a ello y lo debe de enfocar esperemos que podamos encontrar un acuerdo próximamente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea

también desde dos prismas diferentes el primero de ellos dirigido a la sociedad en general en este ámbito nos proponemos fomentar la actividad física por parte de la ciudadanía

para ello en la dirección de juventud y deportes trabaja de manera coordinada con la dirección de salud pública como usted le he interpelado también

en la elaboración de un plan director de actividad física dos mil veinte cuyo objetivo principal consiste en crear una sociedad más activa

ante el consejo vasco de deporte dónde se encuentran representadas diversas instituciones agentes y deportistas

estamos convencidos de que con la adecuada colaboración institucional y aceptación social lograremos que euskadi sea una referencia en la actividad física que realice su ciudadanía propiciando un cambio cultural y social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras personas y en segundo lugar impulsar el deporte de alto nivel e internacional atraer competiciones deportivas de gran interés

y apoyar a nuestros deportistas olímpicos así como a aquellos que no siéndolo cuentan con una gran proyección de futuro usted hablaba de presupuesto el presupuesto del dos mil catorce del deporte son siete coma cinco millónes de los cuales usted

también podríamos hablar de los dos millónes de los deportistas de alto nivel yo creo que todo cuenta aquí no kirolaren bi esparru oso ezberdinak

en sus diferentes ámbitos y continuará otorgando las necesarias ayudas y ofreciendo

tanto a través de infraestructuras y estructuras existentes como a través de un sistema de convocatorias públicas que responde a los necesarios principios de objetividad transparencia e igualdad

gracias señora presidenta señora beltrán de heredia

recoge una inquietud y también pues lo que pretende es propiciar o encontrar cauces para arreglar algo

responsables públicos no funciona bien o debe de ser mejorado ese es desde luego el propósito de esta interpelación que

recientemente alcaldes de municipios alaveses solicitaron al departamento de seguridad del gobierno vasco el aumento

registradas en los últimos meses en viviendas en explotaciones agrarias en almacenes rurales etcétera solicitaban medidas para la prevención de robos en zonas agrícolas y un plan para evitar este tipo de delincuencia que en determinados puntos vulnerables con características especiales

los alcaldes recogían se cogían la preocupación inquietud de la población en este caso fundamentalmente

inquietudes y opiniones y valoraciones que les habían hecho llegar a estos representantes municipales responsables y representantes laborales de la propia policía autónoma vasca los alcaldes de

exigían el aumento de la presencia de la ertzaintza en el territorio

agrícolas consideraban que la actual organización de la ertzaintza deja amplias zonas del territorio alavés sin protección

ejemplos de ellos son en el caso de valdegovía en que las patrullas

que se producen intervenciones en los que la patrulla tarda alrededor de una hora en presentarse en el lugar de los hechos bueno en el caso de la montaña alavesa de illana las patrullas deben acudir desde vitoria ya que la demarcación policial corresponde a la capital

decían que el caso de laguardia es paradigmático ya que se trata de una comisaría que debe atender a una zona extensa que su plantilla está infradotada

y las propias centrales decían han denunciado en público que se han registrado graves incidentes en los que tan solo dos patrullas podían acudir a resolver un problema y ello implica dejar a una persona sola en comisaría ellos exigían escrito la consejería de seguridad que cambie

es un elemento a considerar importante reclamaban una mayor presencia que se comience a ver patrullas de la ertzaintza para que pueda realizar una labor

en las zonas rurales de álava ese es el planteamiento o la reflexión que hacían decían también que querían una ertzaintza que evite robos y que no acuda a levantar el acta cuando ya han roto la cerradura y se lo ha llevado todo expresión gráfica pero cosas así siguen pasando ellos decían que exigían a la consejera de seguridad

en grandes extensiones de terreno con puntos más vulnerables

desocupados parte del año y proponían la creación de patrullas rurales para

de los últimos meses y garantice la seguridad máxima en todas las

bien son constatación de realidades son recoger inquietudes de la población o de los responsables sindicales lo que hacían estos alcaldes

de propuestas concretas e indicaban especiales situaciones y sobre todo indicaban una sensación que les haría acudir al departamento a través de la firma

en ese sentido mi grupo entiende que es importante que se dé respuesta a esa inquietud a esas sensaciones preocupantes que manifiestan los responsables

precisamente de esa sensación de inseguridad y

nosotros le planteamos cuáles son las medidas que va a poner en marcha a partir de esta solicitud municipal y en el inmediato futuro

y para evitar la desprotección en amplias zonas del territorio histórico alavés muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

ha hablado de déficit policial de inseguridad yo la verdad no acabo de entender qué busca el partido popular con este

hablar de inseguridad de la inseguridad que sufre álava frente a algunos delitos concretamente como usted ha aludido la inseguridad que sufre rioja alavesa

de tratar de lograr ciertos efectos de notoriedad política sin reparar en las consecuencias que tiene ello es verdad que los alcaldes del partido popular de rioja alavesa y una representación y el portavoz del partido popular en añana me dirigieron una carta sentido una carta que fue posterior a la rueda de prensa que dieron denunciando esto lo cual ya es sintomático de cómo se actúa pero qué es una oleada de robos señor barrio qué es una oleada de robos que un fin de semana ladrones asalten unas casas en labastida

para denunciarlo eso es una oleada de robos de eso estamos hablando en el parlamento que le roben a uno por supuesto que molesta disgusta preocupa me disgusta a mi me preocupa a mi y también a usted seguro y a todo el mundo y por desgracia esto ocurre ocurren en rioja alavesa ocurre en la llanada ocurren en ayala ocurren en bilbao ocurre en

mire usted en la dirección que mire ocurre pero una cosa es hablar de robos y otra cosa es hablar de oleadas de robos de inseguridad de desprotección

lo cierto es que álava en dos mil trece fue más segura que en dos mil doce

los datos son esos yo entiendo la preocupación de alguien cuando sufre un robo entiendo la preocupación pero también tenemos que ser responsables y tratar los datos adecuadamente en el caso de robos en concreto lo que el código penal tipifica como robos con fuerzas en las cosas o robos con fuerza en cosas en domicilio

también hubo un ligero descenso muy ligero apenas dos décimas usted entendería señor barrio que con esas dos décimas de caída yo

supongo que no supongo que no por tanto yo tampoco puedo entender que haya esta necesidad de generar alarma al hablar de oleada de robos

que puedan tener nuestros ciudadanos y ciudadanas sobre todo si los datos

y los datos de casos investigados no dan motivo para ello a qué viene esto un robo ya se lo he dicho antes es algo que disgusta que genera pérdidas que genera preocupación que genera malestar en los afectados y en su entorno y es un tema que debe preocupar a los responsables municipales y también a los responsables de seguridad y en lo que a mi concierne a la ertzaintza así es y así va a seguir siendo

los alcaldes transmitiendo sensaciones de los sindicatos de qué estamos hablando señor barrio espero que luego me lo aclare

como digo la lógica preocupación en nuestro caso en el caso de los responsables políticos tiene que ir acompañada insisto siempre en lo que proclamamos ser responsables por tanto tiene que ir acompañada de responsabilidad

y conocimiento de la realidad mire en verano de dos mil trece el alcalde de oyón del partido popular

publicaban un comunicado conjunto que decía le voy a decir textualmente

de los vecinos existiendo un contacto permanente y una extensa colaboración entre ambas instituciones un párrafo después decía

de forma incesante en la prevención vigilancia y protección de los vecinos

en tiempos determinados y al ritmo correspondiente

se deduce que vivimos en una comarca tranquila lo que hace que entendiendo la sensación que tienen los vecinos no se justifique la alarma social generada

insisto publicado y difundido en una revista municipal que el ochenta por ciento de la resolución de los delitos tiene su origen en la colaboración ciudadana

ese es el camino la colaboración señor barrio y esa es la responsabilidad que tenemos todos los políticos sean alcaldes sean parlamentarios o sea la consejera no a la alarma innecesaria

nada ha cambiado en los datos de delictividad para quien

para que ahora diga otra cosa para que ahora los alcaldes del partido popular en la demarcación de rioja alavesa y usted aquí en el parlamento

diga que estamos desprotegidos ante una oleada de robos en álava en la demarcación de gasteiz en la demarcación

de laudio no hay más delitos de robo que en otras demarcaciones de euskadi

en los polígonos industriales eso ocupa y preocupa a la ertzaintza todo el espacio

y en algo como le he dicho estaremos contribuyendo a que esos datos

mejores en dos mil trece que en dos mil doce porque al número de patrullas simultáneas

y de organización que estamos llevando a cabo tenemos un mínimo de cuatro patrullas simultáneas durante veinticuatro horas en laguardia y veinticuatro en gasteiz y tres en laudio esto significa que estamos muy por encima en patrullas activas de lo que estábamos en dos mil doce y sabe por qué

hemos primado la seguridad y la protección ciudadana la cercanía la investigación de casos

ninguna de las tres comisarías de álava están por debajo de los ratios que se aplican en el conjunto de la red de comisarías de euskadi y de hecho en el caso de laguardia en concreto

de trece mil quinientos habitantes aproximadamente noventa y cinco estamos por encima de la media de dotación de todo euskadi

a pesar de la extensión geográfica que abarca por delante de otras comisarías como pueda ser la de laudio insisto en que no hay datos para la alarma

y menos desde los poderes públicos en este sentido la actitud del partido popular en esta cuestión yo creo que no está ayudando para nada a la buena imagen que tiene rioja alavesa y así me lo han trasladado otros alcaldes y así se lo hago llegar

también en relación con los robos en las zonas rurales se ha actuado tomando medidas de excepcionalidad y las medidas necesarias para acatar y para hacer frente al problema el problema más grave de robos

se saldó con la detención de una banda itinerante que actuaba en montaña que actuaba en navarra y que actuaba en rioja insisto lo que

los datos de las denuncias presentadas y los datos de los casos investigados no dan motivo para la alarma por tanto no hay que hablar de alarmas innecesarias y no hay que

inseguridad todas las denuncias son motivo como le he dicho antes de atención y de preocupación del seguimiento de la ertzaintza sean en el medio rural

sean en polígonos industriales sean en comercios sean donde sean todas y cada una de ellas por tanto

esta es nuestra responsabilidad y esta es la que vamos a seguir ejerciendo eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea barrio jauna zurea da hitza

pero no se enfade conmigo ni se enfade con el partido popular

tome medidas analice la situación no es una cuestión

política como ha dicho usted no señora consejera no es una cuestión de notoriedad política es una cuestión de preocupación y es una cuestión de inseguridad

cuando el gobierno maneja los datos las estadísticas siempre se pulen

y se la trasladen es que la población está preocupada y es que además los representantes sindicales están preocupados porque se lo han hecho trasladar a los alcaldes

a usted a manifestarle esa sensación lo que yo creo que no está bien es que usted no haya estado con ellos ya con los alcaldes les haya tranquilizado les haya dicho las medidas yo creo que eso es lo que tiene que hacer lo primero después de recibir

si usted considera que esa carta es incorrecta o es errónea o tiene cuestiones que no deben ser así usted es la primera que debía de haber tomado esas medidas debía

y debía de haber estado con ellos y haberles contestado yo creo que era lo

relación institucional de primero de política pero bueno

decía que los representantes sindicales habían dicho lo que habían dicho en relación con las cuestiones que nos ocupan o sea el sindicato erne denunció en septiembre

claramente falta de personal en la comisaría de rioja alavesa ellos decían no lo digo yo sí eso no lo dice

con este parlamentario ni con el grupo al que representa ellos nos decían y nos lo han trasladado y han trasladado a la opinión pública que la dotación

está por debajo de lo acordado y pactado en la rpt lo dicen ellos dicen ellos y usted lo sabrá porque lo habrá oído más de una vez incluso

en septiembre convocaron una manifestación allá en laguardia por la falta de plantilla decían ellos por la falta de plantilla y la falta de seguridad que en este caso lo presenta la comisaría de laguardia que venimos denunciando ellos

en ese sentido hoy he hablado con ellos y qué cómo está la cosa se ha arreglado algo en relación

en septiembre y me ha dicho que no que objetivamente incluso ahora hay un agente menos

señora consejera si le manifestamos o le trasladamos estas sensaciones

si es porque las pone de manifiesto un sindicato

un colectivo de alcaldes que representan a los ciudadanos en una determinada zona y tienen sensaciones de desprotección o de inseguridad pues será usted la que tenga que tomar las medidas la que tenga que

su papel está la relación institucional estar con ellos trasladarles lo que va hacer el gobierno vasco lo que puede hacer el departamento de seguridad para mejorar yo creo que siempre es bueno además trabajar nunca será completa la seguridad efectivamente pues por eso

por lo menos en las formas en este momento ha fallado además

con la cuestión de la carta de los alcaldes trasmitiendo una sensación que forma parte

con la denuncia de falta de personal que realiza el propio sindicato en relación con su implantación en la rioja y en este caso se confirma la denuncia que la policía vasca

lo ha dicho ela esperemos que eso no sea lo que ocurra en las zonas rurales de álava en los próximos tiempos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

pero en cualquier caso usted dice no está bien que no se reúna con los alcaldes mire los alcaldes tienen una relación y usted lo sabe permanente

comisaría de laguardia y tienen una relación insisto permanente y continua con el nagusi de la comisaría de laguardia quien les atiende en cada momento

no solamente les atiende sino que les conoce les entiende

yo aquí le he oído a usted y no sé si venía como portavoz de los alcaldes al final como portavoz del partido popular o como portavoz sindical

no sé qué papel le ha tocado jugar aquí pero en cualquier caso usted decía

otros dicen que esta sobredotada entonces

es que tenemos que basarnos en los datos en los resultados en la eficacia y en la eficiencia

y me ha sorprendido que precisamente dos alcaldes de dos ayuntamientos labastida y

que en labastida así como un treinta y seis por ciento y un veintiuno por ciento en baños de ebro

fueran portavoces de esta preocupación usted me achaca además a mí las formas

de los alcaldes de los responsables políticos la forma de resolverla sea a través de una rueda de prensa

comisaría o en primer lugar a la consejera usted no cree que esa es la forma si realmente buscamos lo que décimos que estamos buscando por eso le hablaba de la notoriedad política que se trata de conseguir con esto

por desgracia evitar robos en espacios abiertos no es fácil es verdad

las zonas rurales probablemente también son más vulnerables

más atención y más intensidad sabemos que estamos hablando de un punto muy delicado muy sensible pero

a veces también en esa rueda de prensa incluso se ponía como referencia la labor que están llevando a cabo los equipos roca

despliegue que tiene la ertzaintza con el que tiene la guardia civil en logroño por hablar de lago cercano no tiene nada que ver

no trabaja específicamente para la zona rural o la zona urbana

desplegada por todo el territorio por toda la comunidad por todo euskadi por tanto el tratamiento es diferente

llegando a contar con seis patrullas en los momentos de máxima actividad pero aun siendo

lo más importante es contar con una estructura de investigación con recursos de apoyo que están disponibles siempre como el apoyo de otras comisarías

los servicios territoriales de investigación o la propia oficina central de inteligencia es ahí donde tenemos que trabajar en la prevención y ahí estamos trabajando intensificando las labores de investigación de casos

y aquí como decía en un principio la colaboración ciudadana es fundamental es fundamental esa colaboración y establecer esas alianzas en ese sentido estamos trabajando señor barrio por tanto

le insistía sabemos del problema y trabajamos cada día por tanto insisto no es cuestión de generar falsas alarmas ni de caer en agravios estériles por supuesto pero

por una parte hay que insistir en esa colaboración ciudadana para denunciar todo lo que hay que denunciar y así facilitar la pronta y rápida resolución y también colaboración ciudadana para la prevención en ese sentido le decía

esta reorganización de la ertzaintza intensificando la investigación de casos intensificación de la investigación para la prevención eskerrik asko

legebiltzarkideok eguerdi on señor consejero buenos días y bienvenido vera usted señor consejero el año dos mil once fue un año de esperanza para miles de ciudadanos

y de una destrucción de empleo también del empleo público en euskadi

y aquí ahora nos centramos en los sanitarios esto era bueno para todos

para unas oposiciones que consolidaban plazas en osakidetza

y probablemente ya todos los parlamentarios aquí presentes puesto que se ha hecho eco la prensa varios días acerca de esto

estas reglas daban prioridad al examen

de cien preguntas sobre mil dadas a los opositores para que se prepararan sino sobre un amplio temario que debían preparar y consecuentemente

en consonancia con dichas reglas de la convocatoria

prioridad a la aprobación del examen en el caso de la ope para entrar fijo el sesenta por ciento era el examen y el cuarenta por ciento

también hay una coincidencia generalizada de que el formato y la expectativa que suponía aprobar la fase de oposición suponía un esfuerzo mayor que el de las otras ope

el resto de quienes habían superado el examen

aunque fuera de forma temporal y quienes no habían aprobado pero acumulaban otros méritos

tampoco perdían la oportunidad si esas listas de sustituciones

pero en este momento las cosas han cambiado por razones que el gobierno no ha explicado y que hoy queremos conocer y son el motivo de esta interpelación

cambiar las reglas de las oposiciones de dos mil once y aplicar

anteriores queremos saber por qué osakidetza y el señor consejero han creado un problema donde no lo había

en un servicio público entre quienes aprobaron las pruebas y quienes no lo hicieron pero tienen otros méritos queremos saber por qué el consejero

introducen malestar en las relaciones entre los trabajadores queremos saber por qué se propician estas situaciones de favorecer espacios de acuerdo y entendimiento no queremos saber señor consejero cuál es su criterio para las futuras ope ya lo preguntaremos en el caso de que se dé esa circunstancia o usted nos lo comentará lo que queremos es que aclare las reglas de la relación entre la administración y los ciudadanos queremos saber

por los criterios de igualdad mérito y capacidad en el acceso al empleo público porque nos ha preocupado mucho

igualando las condiciones de entrar en la empresa pública a las de la empresa privada queremos saber qué tiene que decir a quienes invirtieron

y con unas determinadas expectativas y hoy ven que su tiempo esfuerzo y dinero queda desperdiciado queremos saber qué les puede explicar a quienes dos años y medio después de haber preparado la ope se sienten engañados por eso le preguntamos cuáles son los motivos

sin ningún tipo de acuerdo sindical ni razón motivada que se sepa quiere cambiar los criterios de confección de las listas de sustituciones derivadas de la ope bi mila hamaika

roncal andrea le he traído el escrito de justificación

y se lo voy a leer yo otra vez porque realmente no tiene desperdicio empieza en el primer párrafo diciendo que en el año dos mil once

a la que se presentaron decenas de miles de ciudadanos permítame completarle la información concretamente se presentaron

suspendieron ustedes al sesenta por ciento exactamente

entre ellas seis mil seiscientos treinta y siete enfermeras cuatro mil ochocientos cincuenta y siete auxiliares cuatro mil novecientos setenta y dos celadores

suspendidos qué les preguntaron en los exámenes porque es difícil realmente es difícil de conseguir sigue usted escribiendo

y las reglas establecidas que incluían entre otras cuestiones que quienes resultaran aprobados pero no tuvieran acceso a plaza accedían a una lista preferente para las sustituciones

porque esto es falso señora roncal no se ha leído usted las bases de la ope las bases no ponen nada de esto una reunión del consejo de administración del nueve mayo del dos mil once tómo ese acuerdo no

sigue usted relatando en el tercer párrafo del escrito

por las que se rigió la ope del dos mil once que fueron consensuadas con los sindicatos falso señora roncal falso

puede usted preguntarle a cualquiera de los tres directores de recursos humanos que tuvieron la legislatura anterior en osakidetza que se lo confirmará

en el anteúltimo párrafo que osakidetza ha optado de forma unilateral por cambiar las reglas

y a quien no efectivamente yo ya me he manifestado en la radio y me manifestaré hoy hoy también no es verdad y usted lo sabe

no ha tomado ninguna decisión al respecto y el acuerdo del consejo de administración del año del dos mil once sigue vigente

realmente no he encontrado bien respondiendo a la pregunta concreta que formula en su interpelación y tal y como he dicho públicamente

no ha modificado los criterios de actuación vigentes en materia de contratación temporal

y me estoy refiriendo a los criterios establecidos en la legislación anterior que siguen vigentes osakidetzak ez du indarrean dauden

ahora bien no creo que nadie se extrañe porque es público que desde el inicio de la legislatura como no puede ser de otra forma tenemos vocación

y un ámbito clave es la contratación temporal o no esta usted de acuerdo osakidetzak ez du erabakirik hartu horren gainean are gutxiago

le voy a recordar cuales son los criterios de actuación actualmente vigentes en materia

volvemos a remontarnos al consejo de administración del nueve de mayo de dos mil once

modifica el criterio previo de contratación laboral y establece el todavía actual y vigente acuerdo de contratación temporal que no pensamos cambiar si es que no nos lo reclama una mayoría sindical estableció un sistema de acceso ligado exclusivamente

fijó un orden de prioridad en la conformación de las listas de contratación temporal es decir estableció dos listas aprobados y suspendidos en resumen

acuerda una nueva regulación en materia de contratación temporal eliminando el modelo previo que venía aplicándose sin ocasionar enfrentamientos entre las personas por el puesto de trabajo

y sobre el que existía un amplio consenso y se modifica pese al rechazo

aldi baterako langileak kontratatzeari dagokienez como usted conoce bien

realizado la pasada legislatura no llegó a ser aplicado por ustedes porque los procedimientos de la ope del dos mil once todavía no han finalizado dicho de otra forma ustedes cambiaron la normativa pero durante toda la legislatura anterior

así el actual conflicto de enfrentamiento entre colectivos de aprobados y suspendidos es la herencia

en materia de contratación temporal señora roncal sabe usted muy bien que la realidad está muy alejada del panorama que plantea así en su intervención ha huido de posicionarse sobre el fondo de la cuestión qué debe pesar más los conocimientos teóricos o la experiencia o una ponderación de ambos

si no va precedida de un acuerdo sindical desde principios de dos mil trece en los inicios de esta legislatura a través de reuniones bilaterales con los sindicatos con presencia en la mesa sectorial hemos planteado como es normal la necesidad de revisar entre otras cosas

ha analizado su experiencia de años los resultados

en otras administraciones de euskadi y del resto del estado

para tener el mayor número de elementos que puedan facilitar el debate de la contratación temporal en la mesa sectorial en todo caso

unilateral por parte de la administración del sistema de listas de contratación temporal y ha manifestado que en todo caso su posible revisión estará siempre sujeta a un apoyo por parte de la mayoría sindical representada por la mayoría sindical representada en la mesa sectorial de salud

ante el sistema de contratación temporal son la contratación es un aspecto que debe ser objeto de negociación colectiva con la representación sindical y nosotros siempre lo hemos hecho así los principios

son igualdad publicidad mérito y capacidad en ningún caso vamos a favorecer ninguna medida que implique un conflicto entre grupo de personas sin trabajo estable no lo hemos hecho nunca no es nuestro estilo y veo que usted va por distinta fórmula

como empleo público que es deben tener en cuenta a todos los colectivos y tratar de una manera equilibrada los conocimientos técnicos y la experiencia profesional terminaré como he comenzado osakidetza no ha cambiado ninguno de los criterios de actuación

y priorizará los aprobados en la última ope osakidetzak ez du

un montón y también quizás algo de azúcar porque con tanta actividad seguro que le ha bajado la glucosa señor consejero

satisfechos y usted dice que por seguridad jurídica no va a modificar los acuerdos de no una reunión del consejo de administración de osakidetza no

publicado en boletín oficial del país vasco no una reunión de amigos para tomar café

no desmerezca usted un acuerdo del consejo de administración porque entonces los anteriores y los posteriores no valen nada y digo que me alegro y se alegrarán los opositores de oír que usted va a respetar por seguridad jurídica lo aprobado por el consejo de administración

que tienen que ver con el tipo de ope porque como usted sabe muy bien un sistema de ope

porque todos los opositores tienen las preguntas que se van a realizar no discrimina a los que más tienen conocimientos a los que más conocimientos tienen eso es para que entren como coladero los que ya llevan trabajando mucho tiempo y ese no es el sistema para entrar en las administraciones y mire no me voy a ir muy lejos para decirle en este parlamento en las

la fase de oposición que puede tener varias fases son eliminatorias

solo con los aprobados por lo tanto no presente usted como una cosa absolutamente irrazonable y fuera de juego dar prioridad a los aprobados con respecto al resto es algo absolutamente razonable y lo hacen muchísimas administraciones pero claro usted me dice queremos dar entrada también a los suspendidos y no me parece mal incorpore usted también a los suspendidos

siempre por detrás de los aprobados porque los aprobados han demostrado mayor esfuerzo en la preparación de los exámenes no es un día que tengas un mal día o un mal rato o tengas un parto

no llevan mucho tiempo preparándose para un examen han dado prioridad a la preparación del examen porque saben que se juegan si no una plaza fija la posibilidad de un empleo temporal y usted ha propiciado con su presentación de vamos a ver si valoramos y cambiamos el criterio un enfrentamiento entre la población le voy a decir lo que nos parece lo que usted ha hecho

no se pueden cambiar las reglas de juego cuando el partido está funcionando todavía no ha acabado el partido y ya quiere usted cambiar las reglas del juego nos parece irresponsable

en un responsable público que debería buscar espacios de acuerdo y entendimiento no espacios de enfrentamiento para la población

porque merced a esta iniciativa usted ha concedido la suerte y la gracia de aceptar una reunión con los opositores aprobados

por parte de usted agradezco que dé valor al parlamento

que efectivamente cumpla usted lo que dice sea sensato sea responsable y oiga también va eso en el código ético eskerrik asko

vamos a ver mire señora roncal yo recibí un escrito de los aprobados

lo hemos manifestado varias veces en los medios de comunicación no hemos cambiado el criterio

del responsable correspondiente no me dé lecciones de ope y ética no es el punto para tranquilizar a todas las personas a las que este rumor ha generado una sensación de malestar e inseguridad se lo voy a decir una vez más

kudeaketa parametrorik aldatuko es del todo irresponsable

pretendiendo generar malestar e incertidumbre con un tema muy delicado como es el puesto de trabajo el sesenta por ciento

suspendieron luego quedarán en la llamada segunda lista que en muchas categorías

las enfermeras los técnicos de rayos no es el parlamento tienen pocos sitios de trabajar fuera de osakidetza no son profesiones donde fuera de osakidetza hay mucho mercado del total de los tres mil cuatro médicos que se presentaron

para concretar un poco más le daré algunos ejemplos el cuarenta y siete por ciento
de los médicos de familia isiltasuna mesedez denontzako el ochenta y uno por ciento de los psiquiatras

de los médicos de urgencias se hace difícil de pensar que profesionales con seis años de formación universitaria

con cuatro y cinco años más de formación postgrado

no sean capaces no de tener plaza que no puede tener todo el mundo pero de aprobar un examen dónde se evalúan conocimientos técnicos del total de

que buscan un puesto de trabajo se presentaron a la ope y suspendieron seis mil seiscientos treinta y siete

trabajadores sociales se presentaron ochocientos setenta y siete suspendieron setecientos cincuenta el ochenta y ocho coma cinco por ciento no seguiré dando datos

para valorar la dificultad

bajo la actual normativa de contratación temporal y van a quedar en la lista dos en cualquier caso señora roncal el las personas que aprueben el examen y que esperan a acceder a algo tan preciado

y que merecen todos mis respetos todos y ojalá tengan ustedes trabajo estable no debe estimularse ni por mí ni por usted yo voy a intentar no hacerlo nunca pero tenga la seguridad de que este malestar no va a ser el único problema

y del cambio en la normativa de acceso al trabajo temporal que ustedes

no se convierten en realidades por más que nos la repita o las grite a los cuatro vientos

es estupendo para usted se la deseo a los que tenemos hoy las responsabilidades de gobierno nos va a tocar trabajar para las personas

que no enfrenten a colectivos de nuestra sociedad especialmente en estos tiempos de crisis y hablando de trabajo temporal y ojalá seamos capaces de darles trabajo estable

también saludar a las opositores que están hoy aquí así como los que nos siguen en la web la verdad es que mi intervención va a ser bastante más breve porque es una pregunta y es un formato con un tiempo más reducido pero sí que tengo que decir que salgo un poco atónita porque me ha dado la sensación de que al final

y yo creo que a un cierto espectáculo para las personas

este debate nosotros siempre preguntábamos por una cuestión concreta y queríamos saber con qué criterios se estaba actuando ante las noticias

de la posibilidad de elaborar una única lista de la ope del dos mil once y por lo tanto modificar

al que se ha hecho referencia nos dice el consejero que no ha tomado ninguna decisión

nos alegramos en el sentido de que esperemos que si ustedes toman la decisión

criterios y nosotros también entendemos que sería modificar las reglas de juego a mitad del partido se haga con el suficiente consenso y que las cosas se hagan

los aprobados pero retomo con el inicio de mi intervención asisto bastante atónita

intención de modificarlo señor consejero entonces no entiendo el revuelo que se ha formado

yo creo que usted ahí también como consejero del departamento de salud tendrá que hacer una reflexión

que si aquí no se ha tomado ninguna decisión no se van a modificar los criterios se va a hacer por consenso y va a seguir vigente

pues las cosas no se han hecho muy bien señor consejero usted debería de hacer una reflexión reunirse con los afectados
y tratar de que las aguas vuelvan a su cauce nada más y muchas gracias eskerrik asko garrido andrea

es verdad que se llamó llamó concretamente la directora

jurídico económico y servicios generales del departamento de salud y llamó si no recuerdo mal si no fue la semana pasada fue la anterior

y había cincuenta y dos mil presentados luego no me ha parecido un volumen

y necesidad de trabajo que la gente le preocupe lo que sí ha habido es un borrador que se ha planteado en la mesa sectorial

los temas de contratación temporal nada más

se van a respetar los criterios y principios que impulsaron la ope del año dos mil once salvo que hubiera sindical mayoritario que sugiriera lo contrario vamos a priorizar las personas que aprobaron la ope del dos mil once y trabajaremos

mucha gente que no ha tenido la

pueda paliar la pérdida de trabajo en un escenario

aunque la convocáramos inmediatamente eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

bueno yo señor consejero volver a apelar a

responsabilidad como consejero de salud en este caso entiendo que ya tenemos

ha causado un malestar una cierta preocupación en los aspirantes que aprobaron la ope del dos mil once

el acuerdo de nueve de mayo de dos mil once pues yo creo que usted lo que tiene que hacer es reunirse con estas personas parece ser que va a haber una reunión no sé si estaba ya fijada o se ha fijado a raíz de estas iniciativas en el parlamento sí es así pues bienvenida

en el parlamento tienen su efecto y desde luego yo creo que hay que

hay en este asunto yo creo que cuando hablamos de oposiciones estamos hablando al final de puestos de trabajo

que puede llevar tiempo en osakidetza trabajando en la sanidad pública vasca trabajando gente con más o menos tiempo en la sanidad pública trabajando pero sin duda detrás

ope a un proceso de selección hay un esfuerzo muy importante y yo creo que todo eso

por lo tanto las decisiones que se tomen tienen que ser ponderando muchas cosas y desde luego con consenso

evitando hacer anuncios que pueden causar un revuelo que al final

que no lo haga usted tampoco nada más como usted conoce bien

es un ámbito fundamental de las relaciones laborales de las empresas en este caso fundamental de las administraciones públicas su ámbito de negociación es la mesa sectorial recibiremos a las personas que han participado en la ope siempre y cuando no recibamos

como comprenderá usted y en esto no son una entidad legalmente reglada de relación laboral

y el ámbito es la mesa sectorial así lo hemos hecho siempre eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

creo que se ha confundido de instrucción la instrucción por la cual usted me ha preguntado

por la que garantizábamos el médico de atención primaria a las personas sin recursos en la comunidad

es del cuatro de febrero y va dirigida a las personas de la comunidad autónoma de euskadi que no teniendo aseguramiento público

mediante el pago de la correspondiente contraprestación económica en estos momentos en euskadi estos no son los inmigrantes no tienen acceso a la instancia sanitaria pública por haber quedado

un pequeño colectivo compuesto por personas empadronadas en euskadi que declararon en la renta del dos mil doce ingresos superiores

ni propia ni están en situación de alta o asimilada a la seguridad social que es a la que se refiere esta instrucción no son perceptores de ninguna otra prestación

u otros de similar naturaleza ni son desempleados que han agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza tampoco son personas que han acreditado la condición de asegurado con cualquier otro título ni afecta

a quién afecta esta instrucción a rentistas con ingresos superiores

a profesionales liberales no dados de alta en la seguridad social

sin aseguramiento público al no tener ninguna de las condiciones mencionadas anteriormente colectivos muy minoritarios en este país

oso kezkatuta zaudetela pertsona horiek pairatzen ari diren egoerarekin desde luego no relacionamos esta instrucción con personas que sufren nuevos copagos

el sistema sanitario público pueden y deben contribuir a

sobre todo si se benefician de él en euskadi los inmigrantes tienen acceso a la sanidad pública

ciento catorce barra dos mil doce de la legislatura anterior y el posterior desarrollo normativo que hemos hecho en esta legislatura eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna blanco andrea

confundido de instrucción lo que no hemos hablado ninguno de los dos ha aparecido son las declaraciones que hizo usted ayer sobre este tema sobre el tema al que yo me refería sobre la resolución del tribunal superior de justicia del país vasco que es cierto que les gustará a ustedes la orden pero a nosotros desde luego no nos gusta ni nos ha gustado nunca y siempre lo hemos dicho ni nos gusta esa orden ni nos gusta el decreto ciento catorce porque nosotros seguimos con el mismo tema y es que nos parece

que se quedan fuera del aseguramiento sanitario que no tienen un año de empadronamiento no están recibiendo la atención como la tienen que recibir sin más usted decía ayer que le parece una herramienta eficaz me refiero al recurso del tribunal superior de justicia y que es una garantía incuestionable bueno esperemos

universal sanitaria porque entre otras cosas estarían ustedes incumpliendo una proposición no de ley una enmienda de transacción que se aprobó en este pleno

blanco andrea creo que me acaba de cambiar la pregunta pero bueno

primera hora nosotros apostamos y trabajamos por un sistema sanitario público universal y de calidad para todos los ciudadanos de euskadi

es una herramienta útil porque ha permitido que a todas las personas

estén empadronadas o no puedan tener atención primaria a través de un médico de familia navarra comunidad próxima optaron por otra situación más parecida al pase foral y ha sido suspendido constitucional nosotros buscamos dentro del ordenamiento jurídico